una patrulla al centro de mando la plaza donde se realizó aquel día la carga estaba tranquila no se veía ningún incidente estaba llena de gente y en esas condiciones era imposible actuar

desproporcionada desaconsejada se puede considerar accidental o hay algo más

que el consejo de europa ya había solicitado al gobierno vasco que no las emplee es accidental es accidental el empleo de estas armas eufemísticamente denominadas menos letales cuando está demostrado con otros casos anteriores precedentes como el de rosa zarra que estas resultan al final ser letales tal y como cuentas testigos cuando

solicitaran una ambulancia porque había una persona herida estos les recibieron a porrazos

dificultaron el acceso de las ambulancias es esto accidental una situación que cuadra con un delito de omisión del deber de socorro es accidental

sostienen que se dispararon salvas sin proyectil o en el caso de que se lanzara alguna pelota esta se lanzaría contra el suelo

incluso los hechos la realidad las circunstancias de lo sucedido se puede considerar accidental es accidental el cierre de filas corporativo

al procedimiento judicial en torno al material empleado a los protocolos de registro de redistribución de materiales a la identidad de los escopeteros emplear el término accidental por el actual director de la ertzaintza señor gabilondo

en similares términos no es sino reducir

la responsabilidad del cuerpo de los agentes transgresores de los mandos que dieron la orden de los políticos que entonces no quisieron adoptar

fue todo esto accidental señora beltrán de heredia eskerrik asko arzuaga jauna jaurlaritzaren ordezkariak

lehendakaria desde el departamento

compartimos las opiniones expresadas por el director de la ertzaintza

compartimos la firme opinión de que en aquel operativo nadie tuvo intención de causar la muerte de iñigo cabacas

y ajustarnos a la realidad de lo dicho para no alimentar más falsas interpretaciones y polémicas y sobre todo para no generar más dolor a los que ya están sufriendo bastante la muerte de iñigo en el contexto de una entrevista radiofónica efectivamente

técnico del operativo policial no calificó jurídicamente

ni emitió ningún juicio de valor sobre lo que la instrucción judicial puede y debe aclarar

la que debe esclarecer los hechos concretos que ocurrieron aquel fatídico día cinco

establecer asimismo las posibles imputaciones y las responsabilidades y desde luego

desde el departamento de seguridad y desde la propia ertzaintza acataremos analizaremos y asumiremos las resoluciones y las responsabilidades que se deriven de la instrucción judicial

señora beltrán de heredia me dice que no había voluntad solo faltaba imagínese

que tienen voluntad homicida contra seguidores de un equipo de fútbol yo creo que frivoliza

de hechos que configuran un homicidio imprudente por supuesto que no hubo una voluntad pero sin embargo lo que sí que hubo

que una carga así podía comportar y aún así se tuvo voluntad en realizar la carga quiero traerle unas palabras de joseba nafarrate realizadas ayer en unas jornadas en recuerdo a iñigo cabacas en las que él mismo joseba nafarrate padre de xuban

son doblemente ofensivas por inmorales y porque está señalando al juez una posible interpretación de los hechos esto es una desgracia para la ciudadanía la muerte de iñigo fue un homicidio y solo espero que algún día

eskerrik asko este es un tema grave

el dolor presente y futuro de la familia de iñigo de los padres de iñigo

todos tenemos esa responsabilidad todos y esta ha sido mi gran preocupación desde que asumí la responsabilidad como consejera de seguridad y va a seguir siéndolo

y en este sentido señor arzuaga no voy a caer

al erigirse defensor de los defensores de la sensibilidad de las víctimas algunos deberes ya le quedan por hacer y por cumplir en ese terreno también su responsabilidad política

le recuerdo cuando yo accedí a la responsabilidad del departamento el caso cabacas

más de ocho meses en sede judicial y les insisto será

la que debe aclarar lo que ocurrió será por tanto la resolución judicial la que deba establecer las responsabilidades las imputaciones a cada cual no es su sensibilidad ni su nuevo modelo policial

en este tema y en otros muchos la investigación llegará a su fin y arrojará unas conclusiones a partir de ahí todos sabremos a qué atenernos

nadie e he dicho el director de la ertzaintza no emitió juicio

ustedes con la manifestación que acaba de hacer aquí sí la está haciendo esa es la gran diferencia

la investigación judicial llegará a su fin arrojará unas conclusiones a partir de ahí todos sabemos a qué atenernos

las responsabilidades que nos correspondan yo comprendo que los padres de iñigo y manuel nos reclamen que hagamos todo lo posible que hagamos todo lo posible todo lo que está en nuestra mano para esclarecer el hecho lo entiendo y lo entiendo que nos exijan
y en eso estamos trabajando desde el departamento de seguridad desde la propia ertzaintza eskerrik asko beltrán de heredia andrea denbora

señor lehendakari el pasado quince de marzo esta parlamentaria le hizo una pregunta muy concreta sobre la previsión de compensar a los colectivos vulnerables

a implantar el copago farmacéutico usted señor lehendakari utilizó su tiempo para recordar

a esta medida y eso está bien pero no contestó a lo que le preguntamos al contrario

en su último turno cuando esta parlamentaria ya no tenía posibilidad de respuesta me preguntó

y cito textualmente si ayuda en algo que sigamos trayendo al parlamento este tema

y agregó una reclamación de prudencia que sinceramente aún los socialistas no entendemos por qué pero yo le voy a señalar una cosa creo

y su grupo traerá a este parlamento este y cualquier otro asunto que considere de interés porque son los grupos parlamentarios

para ejercer la función de control al gobierno y porque en este tema concreto hablamos de una decisión como es la aplicación del copago que afecta

pero que en caso de implantarse la medida deberán abonarla pero más aún

y a través de los medios de comunicación hemos conocido y confirmado por fuentes de su gobierno que tienen ya planificada la implantación del copago

por ello ahora mismo no le pedimos que nos recuerde su posición con respecto al copago lo que le pedimos es que informe a esta cámara y a través de ella

que se van a poder ver afectados por esta medida cuál es la fecha
en la que prevé que empiece aplicarse este copago eskerrik asko roncal andrea jaurlaritzaren ordezkaria den darpón jaunak dauka hitza

lehendakari jauna egun on como todos ustedes saben este gobierno y este consejero

en numerosas ocasiones en contra de los copagos y en particular del incremento del copago farmacéutico existente tanto en el fondo como en la forma de aplicación la norma que supone la implantación del copago farmacéutico

va en contra de las competencias autonómicas previstas en el estatuto autonomía de gernika y vulnera también

además dadas sus características tenemos absolutamente claro que este sistema de copago no es fiscalmente justo con respecto a su aplicación en la comunidad autónoma volvemos a decir algo que es de sobra conocido

derivada de un auto del tribunal constitucional que dejó en suspenso determinados artículos del decreto ciento catorce barra dos mil doce del gobierno vasco

a la población asegurada por sistema sanitario de euskadi no obstante desde que el gobierno tomó posesión se iniciaron los trabajos

una solución que de soporte al copago o al incremento del copago farmacéutico con dos premisas que la solución

el desembolso por adelantado de cantidades por encima de los topes de aportación

sea lo más sencilla posible de gestionar tanto para las oficinas de farmacia como para los servicios del departamento de salud que deben tomar parte en el proceso bajo estas premisas estamos desarrollando un modelo organizativo

conocer el tipo de aportación en cada farmacia que corresponde a cada persona aseguradora y registrar las aportaciones efectivas correspondientes a cada receta dispensada y al mismo tiempo controlar los límites mensuales máximos de aportación para evitar el adelanto del dinero

como seguro conoce poner en marcha el sistema es complicado

con unas fechas aproximadas que el gobierno y su portavoz ha dicho en ocasiones no obstante cuando lo tengamos preparado a una fecha cierta lo comunicaremos en euskadi nuestro sistema permitirá que solo se copague la cantidad estipulada mensualmente ni un céntimo de euro más

entendemos que hay que acatar las decisiones judiciales solo si me permite

medidas informáticas para que los datos fiscales de los ciudadanos vascos estén en las farmacias de todo euskadi y haya tanto problema para que estén en las distintas haciendas forales en cualquier caso en la comparecencia de usted consejero de salud hace poco más de dos semanas para dar cuenta de los presupuestos de su departamento

dijo que el proyecto no contempla el impacto económico del copago

y las propias oficinas de farmacia con los farmacéuticos una aproximación a la aplicación del copago es cuando menos llamativo porque sí tiene incidencia presupuestaria por lo menos en los ingresos

por haber contado a los medios lo que no cuenta aquí nosotros defendemos la importancia de la prensa para difundir la gestión política pero imagina a un ciudadano o ciudadana de recursos limitados necesitado de medicación

este ciudadano le escucha a usted el discurso de rechazo al copago que hoy ha repetido aquí pero un día compra el periódico y lee que a partir de junio

haga usted ese ejercicio de empatía y dé un paso más transforme esa empatía en acción política dígale a ese ciudadano o ciudadana desde cuándo va a aplicarlo y que desde ese momento usted arbitrará medidas para compensarle no solo para no cobrarle en exceso

nosotros hicimos la presentación del presupuesto y dijimos claramente

una fecha exacta de aplicación no contemplábamos en ese presupuesto reintegro que pudiera proceder del copago farmacéutico eso es lo que dijimos y eso es el presupuesto que hemos presentado desde el principio este gobierno

que precisaríamos de un período aproximado de seis meses para desarrollar una solución que ofreciese garantías a los ciudadanos insistimos que

o nada a la sostenibilidad del sistema vasco de salud lo pondremos en marcha en un período aproximado de seis meses desde que llegamos al gobierno y lo comunicaremos oportunamente

quedan dos semanas para el debate de las enmiendas a la totalidad en este pleno y el gobierno hasta el momento capaz de concitar los apoyos necesarios en un momento tan importante para la economía vasca

en la aprobación de los presupuestos ha mandado pedir responsabilidad a los demás la que no queda clara hasta el momento es la suya la suya propia por eso le pregunto

para tratar de alcanzar una aprobación de los presupuestos resucitar institutos

o centrarse en buscar los apoyos necesarios para la economía vasca eskerrik asko

estoy dispuesto a desarrollar todas las acciones necesarias para alcanzar la aprobación de los presupuestos todas y lo sabe usted

creo contar con el aval de las acciones ya realizadas con este objetivo

de presidente del partido nacionalista vasco hasta el quince de diciembre y lehendakari desde aquella fecha hasta hoy

y todas las señorías a los próximos días una vez del cierre del cierre

primero propiciar el acuerdo del consejo vasco de finanzas de octubre en el que se establecía

segundo aprobar en tiempo record las directrices económicas del presupuesto que no había aprobado el anterior gobierno tercero adelantar a los grupos las líneas generales del presupuesto antes de su aprobación por el gobierno cuarto mantener una reunión de trabajo con usted

en la que le presenté las limitaciones del marco general de nuestra propuesta quinto

evitando una actitud de reproche hemos sido menos críticos con la gestión económica del anterior gobierno de lo que usted mismo lo fue sexto

una labor encomiable del consejero de hacienda y finanzas y su departamento

séptimo respetar la limitación del déficit en el cero coma siete por ciento

y cómo estableció esta limitación constitucional octavo retomar la negociación para que todas las instituciones cuenten con presupuesto aprobado todas el canon de vitoria gasteiz a solicitud suya personal noveno retirar la propuesta de estimación de ingresos adicionales del consejo de finanzas del pasado mes de febrero podría ser aprobada y la retiramos en aras del consenso sí quiero reconocerle a usted que al menos usted

y todos los consejeros y consejeras han presentado al detalle su presupuesto

ha mantenido ya dos rondas de trabajo con todos los grupos he hecho y haré
señor basagoiti todo lo posible para aprobar el presupuesto de este año eskerrik asko lehendakari jauna

pero creo que no ha concentrado ni ha

de manera concreta qué actividades o qué actuación de liderazgo ha hecho usted para aprobar este presupuesto lo que ha hecho su gobierno es delegar en el consejero de hacienda pero es que usted también puede asumir esa función y yo creo que la obligación que tiene usted

a dar tres cifras etéreas sin ninguna concreción es que eso no es

de liderazgo yo creo que su cargo le exige mayor iniciativa política concreta es preocupante que el gobierno que usted dirige cuatro meses después

sigue dando muestras claras de desorientación en muchos temas sin rumbo definido

de una cabeza visible en asuntos tan cruciales como el presupuesto por eso yo le digo con todo el respeto que si de verdad quiere sacar adelante este presupuesto

necesita unas cuentas para afrontar este ejercicio tan duro y tan difícil mójese

salga del despacho convoque a los partidos ejerza

ahora es fundamentalmente la de que euskadi tenga un presupuesto demuestre con mucho mayor énfasis que unas cuentas no espere a que otros hagan el trabajo por usted saque carácter y demuestre de verdad que hace falta estos presupuestos señor

seguir diciendo generalidades sobre el presupuesto o actuar

tiene dos opciones o seguir como están haciendo

de ese movimiento demuestre ese carácter político actúe por favor con responsabilidad y asuma la iniciativa para buscar los apoyos que el presupuesto necesita creo que esta actuación requiere responsabilidad mucha responsabilidad poca delegación en otros consejeros on todos mis respetos y mucha responsabilidad

los apoyos que hoy no ha conseguido por eso le propongo que se mueva que acuerde reuniones que ponga documentos encima de la mesa que demuestre que de verdad cree que euskadi necesita un presupuesto en una crisis económica como la actual la responsabilidad de un posible fracaso a la hora de aprobar estas cuentas la pagará euskadi toda euskadi pero la culpa será suya solo suya eskerrik asko

que por un momento no mire ni a lo que es el ejercicio de este lehendakari ni de sus consejeros ni de la delegación que el lehendakari pueda hacer en sus consejeros

ninguna duda y no le pido que mire al gobierno solamente sino que pido que mire al país como hemos mirado otros durante los últimos años cuando se ha tratado de no impedir los presupuestos en las instituciones y yo solo pido una cosa realismo yo no he escrito la cifra

estoy dispuesto yo personalmente a analizar su reparto estoy dispuesto a acordar como he dicho también el destino prioritario de hipotéticos

que nadie me pida que destine la deuda a algo que no sea inversión no estoy dispuesto a comprometer más gasto del que nos podemos permitir y no podemos gastar más de lo que tenemos

de que podremos llegar a un acuerdo sobre unos mínimos que permitan unos presupuestos adecuados a los condicionantes

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos buenos días señores consejeros señor lehendakari lo cierto es que ustedes nos han presentado un proyecto

y ajustes y un proyecto de presupuestos que no sirve para incentivar la actividad económica y para crear empleo y por lo tanto para poner las bases de un presente y un futuro mejor creo que incluso ustedes mismos lo han reconocido lo cierto es que es un proyecto de presupuestos y basta con estudiarlo que lamina de hecho todas aquellas partidas

con el empleo con la tecnología con la innovación con el desarrollo con la internacionalización es decir es un proyecto de presupuestos

con aquellas partidas que son absolutamente indispensables para poner la base de nuestro presente y de nuestro futuro es un proyecto de presupuestos

la dotación de las becas no universitarias se reduce en un sesenta y dos por ciento ikerbasque prácticamente reduce su presupuesto en un quince por ciento

un cincuenta por ciento las becas de excelencia han desaparecido

del treinta por ciento los centros de investigación de excelencia se recortan en casi un veinte por ciento la partida dedicada a la tecnología se reduce en un treinta por ciento

todas aquellas partidas relacionadas con la salida de la crisis y nos parece un gravísimo

y nuestro futuro lo cierto es que en los últimos tiempos los diferentes gobiernos de españa han hecho básicamente lo mismo

por qué de esta decisión que nosotros consideramos absolutamente incomprensible gracias eskerrik asko maneiro jauna

de la demanda permanente del déficit y del endeudamiento rampante no es el tiempo que vivimos vivimos el tiempo del realismo del rigor y por tanto de la elección de la elección con nueve mil trescientos dieciséis millónes frente a diez mil cuatrocientos millónes del año pasado

y la sanidad la educación los servicios sociales y el apoyo a los emprendedores y la ayuda al comercio

y el apoyo a la creación cultural y tantas cosas dena da garrantzitsua bai baina orain aurrekontu bat onartu behar dugu

efectivamente señor lehendakari lehentasunak eso es lo fundamental qué es aquello que es prioritario y qué no es prioritario y a día de hoy es fundamental y ayudar a las becas la tecnología el comercio la ciencia la investigación eso es prioritario para los ciudadanos vascos sin embargo en este proyecto de presupuestos

muy sustancialmente de manera muy importante y esto va a condicionar nuestro presente y nuestro futuro efectivamente ustedes hablan permanentemente de las estrecheces presupuestarias y se lo recordamos

estas estrecheces presupuestarias si se hubiera acometido una reforma fiscal en años anteriores y ustedes se opusieron si se hubiese puesto en marcha un plan conjunto de lucha contra el fraude fiscal y ustedes se opusieron si se hubieron cerrado los chiringuitos durante los últimos años y ustedes se opusieron

el entramado institucional vasco para evitar duplicidades y ustedes se opusieron pero incluso con este nivel de gasto lo cierto es que hay que priorizar unas cosas sobre otras y ustedes laminan todo lo relacionado

y mantienen determinadas partidas identitarias y esta es la realidad de los hechos y nos parece un grave error porque va a lastrar nuestro presente y nuestro futuro es decir este gobierno prefiere mantener embajadas este gobierno prefiere

que sacarla de la crisis y esto nos parece ciertamente

es fundamental para la salida de la crisis gracias lehendakari eskerrik asko maneiro jauna erantzuteko lehendakari jaunak dauka hitza

izango da la ciencia la investigación y el desarrollo es una prioridad para nosotras y para nosotros es una inversión estratégica en una red profesional

le voy a decir más es tan importante para nosotras y para nosotros que hemos garantizado el mantenimiento

de todos los proyectos en marcha todos señor maneiro todos los proyectos que estaban en marcha el pasado año se mantienen

todos señor maneiro cómo lo vamos a conseguir con una optimización de los recursos haciendo un uso más eficiente de los mismos y orientándolos a obtener el máximo resultado estamos obligados a un mayor seguimiento y evaluación de las inversiones realizadas

y así lo vamos a hacer pero insisto en lo importante todos los proyectos que estaban en marcha el pasado año lo siguen estando este año todos están en marcha no podremos abrir nuevos proyectos este año pero lo haremos en la visión del conjunto de la legislatura beraz maneiro jauna

gakoa aurrekontua onartzea da horrela erakusten da benetako lehentasuna y si queremos aprobar el presupuesto señor maneiro

este proyecto de presupuestos señor maneiro no va por donde usted dice ni es ni es ninguna otra cosa que usted quiera criticar este presupuesto es realista hablemos del presupuesto y ya hablaremos de otras cosas que dice usted
que afectan también a este presupuesto en el futuro eskerrik asko lehendakari jauna gai zerrendako seigarren puntua galdera

petróleos del norte sa enpresak inauguratutako fuelolioaren

baldintzak errespetatuz sí señor maeztu esta ha sido una inversión importante para euskadi

una inversión que contribuye a la reactivación económica de meatzaldea

e importancia de la empresa que ha acometido este proyecto es una inversión que contribuye al mantenimiento del empleo y que ha ofrecido una oportunidad de creación de nuevos empleos

que genera confianza tenemos que invertir con confianza y si no se invierte con confianza en este país no volveremos a recuperar el desarrollo que hemos conocido con estas

otros proyectos también en el ámbito de la energía eskerrik asko lehendakari jauna

amildegira eramaten gaitu inongo zalantza barik no hay que leer mucho ni hay que saber mucho

para ver que estamos en un momento donde la producción del petróleo ha llegado ha tocado techo

del petróleo seguir apostando por este tipo de energías es llevarnos

y energético vasco además y teniendo en cuenta

la fuente de energía junto con el carbón que mayor incidencia tiene en el cambio climático esas apuestas que hacen sobre el papel como en la estrategia energética

de este país de apostar por las energías renovables de comprometerse en la reducción de las emisiones a la atmósfera y en el cambio climático

del veinte por ciento de producción en energías renovables se consigue apostando

y por el coque eh bildu lo tiene claro no

y el medio ambiente se respeta y la cultura del ahorro la eficiencia y el uso racional de la energía se impulsan cumplimos y vamos a cumplir la estrategia energética de euskadi dos mil veinte que es la que también marca lo que es la actuación

ahora bien me habla de cambio climático emisiones de ce o dos le voy a dar un dato que quizás desconozca usted

es equivalente a las emisiones producidas por el tráfico en día y medio en donostia

si su grupo quiere cerrar esta planta de coque si cumple con la normativa y ayuda al desarrollo de euskadi estaría dispuesto usted a prohibir el tráfico en donostia no exija a los demás los compromisos que no están dispuestos a asumir ustedes eskerrik asko

nosotros considerábamos que evidentemente era muy importante que el lehendakari hubiera asistido a la inauguración

de petronor porque evidentemente nosotros sí que estamos de acuerdo con mantener mil empleos directos sí estamos de acuerdo con mantener más de seis mil empleos indirectos y sí estamos de acuerdo

mostrar la consideración necesaria a alguien que con sus impuestos al año

financia directamente el cinco coma cinco del presupuesto de este gobierno incluso el que nos ha presentado este año y por lo tanto

en esa planta y para el mantenimiento de esa planta incluso de la propia empresa petronor en el pasado yo tengo que decirle señor lehendakari que no dudo de su dedicación

que no dudo de su apoyo y del de su partido a la planta de petronor no tengo ninguna duda porque además

pero usted tendrá que reconocernos que hemos asistido a un culebrón propiciado

pues por entre otras partes por su propio gobierno hemos asistido al culebrón de que

por una incompatibilidad de agendas hemos oído múltiples excusas

asistimos algunos a esa inauguración el portavoz del gobierno

que evidentemente sus motivos tendrá y supongo que son muy razonables pero tampoco el portavoz del gobierno trasladó el mensaje del lehendakari aquel día sino que hizo el discurso de los logros del gobierno que logros hasta la fecha

y por eso es por lo que nosotros le hemos hecho la pregunta que le hemos hecho es decir

han organizado ustedes mismos con sus argumentos

es por lo que queremos saber su respuesta muchas gracias eskerrik asko damborenea jauna jaurlaritzaren

intentaré responder a todos intentaré responder empezando por decir que creo que el portavoz del gobierno habló no de los logros del gobierno sino de las apuestas del gobierno vasco

en la anterior pregunta parece que me asiste el don de la ubicuidad critica porque se me critica por una cosa y por su contraria a la misma cuestión lo he dicho

conozco la importancia de la inversión de petronor desde el origen desde el momento en que me correspondió tomar decisiones en la parte que me correspondía y de manera compartida decisiones difíciles para impulsar este proyecto tuve que emplearme a fondo y anteponer el interés de esta inversión

un alto coste político por ello no fue fácil y la empresa petronor conoce la importancia del apoyo que desde mi responsabilidad

efectivamente y yendo a otro ámbito que usted ha tocado no participé en el acto de inauguración de esta planta y no lo hice

o lío generado por el gobierno vasco no no no lo hice por razones de agenda sí

porque la recepción de una invitación registrada dieciséis días antes del acto dieciséis días antes del acto en una semana en que no estaba obligado

inconciliable con otros compromisos personales pero tan o más compromisos señor damborenea en cuanto tuve conocimiento de la importancia

y ante mi imposibilidad lo comuniqué directamente a los organizadores excusé mi asistencia y expliqué los motivos de índole personal y familiar que impedían mi presencia comuniqué la composición de la representación del gobierno en el acto

sinceramente señor damborenea no llego a entender dónde está el problema después de lo explicado no tengo constancia de que mi ausencia haya repercutido negativamente en nada

o el de mi gobierno a esta empresa y a la inversión realizada un respaldo personal e institucional que seguiremos manteniendo en beneficio siempre de euskadi

señor lehendakari usted además de lehendakari es el representante

yo no dudo de su apuesta y su apoyo a petronor y en este caso

en la planta que era repsol evidentemente también venía el príncipe de asturias yo no sé si es que los domingos de resurrección

a unos cuantos dirigentes de su partido y de repente desaparecen

es evidente que si usted no entiende que es un error no haber estado ese día el lehendakari que el gobierno es una institución

se nos ha recordado y se nos ha dicho que a ver qué críticas hacemos al lehendakari que el lehendakari es una institución efectivamente el lehendakari es una institución

cuando viene la institución que representa a la jefatura del estado en este caso la corona que también se merece su respeto y ya sé también que usted

si usted no es capaz de reconocer que se equivocó por no asistir pudiendo hacerlo comete usted

máxime cuando usted mismo y su partido por cosas similares

ya me he explicado suficientemente y de verdad que no quiero hablar no quiero hablar o hacer otras consideraciones sobre este particular y prefiero quedarme en haber expuesto claramente la razón de mi ausencia y no quiero hablar y a buen entendedor pero

merece un respeto público y privado de la misma forma que asumo plenamente que el lehendakari está sujeto a una responsabilidad pública y que su vida personal o familiar no pueden ir en menos cabo de esta responsabilidad y creo que la cumplo primero con el parlamento y segundo con la sociedad en base a un determinado comportamiento considero que en este caso este menoscabo que usted plantea no se ha producido lo importante es

presidenta señor lehendakari en su comparecencia el pasado veintiuno de marzo ante ciudadanos vascos

a superar los enredos políticos para alcanzar los acuerdos que este país necesita y nos entró una duda que pensamos que usted nos puede aclarar

cuando hablaba de enredos políticos que dificultan los acuerdos para empezar por los acuerdos a qué se compromete usted señor lehendakari para alcanzar esos acuerdos porque hasta la fecha no conocemos ninguno que usted haya hecho posible

y en cuanto a enredos no sabemos qué es para usted un enredo político decir que no a unos presupuestos como los que su gobierno ha presentado en esta cámara

el partido socialista el partido popular toda la oposición en su conjunto

que el anterior gobierno no presentó las directrices presupuestarias cuando sabe usted perfectamente que lo hizo

del consejo vasco de finanzas porque eso sí son enredos y supongo que usted incluía en esa expresión a su propio partido político

miembro del partido nacionalista vasco porque supongo que no nos querrá decir que por el hecho de ser usted lehendakari con todo el respeto que se le merece pase a estar por encima de la política y de las decisiones o no decisiones hasta el momento

a otros anteriores señor pastor un tiempo de crisis pero también un tiempo de oportunidad lo estoy intentando subrayar una y otra vez un tiempo en el que la sociedad vasca

en la concertación más que en la confrontación en tratar de desenredar los conflictos más que enredarlos más y más en superar los desencuentros y abonar los acuerdos creo que es suficiente con remitirnos a declaraciones que luego no se corresponden con los hechos con los hechos en las relaciones políticas y en las relaciones

en mi intervención y esto es desde luego lo que intento eskerrik asko eskerrik asko lehendakari jauna pastor jauna zurea da hitza

el tiempo de crisis no se instaló en euskadi el quince de diciembre

en el tiempo anterior no se pueden decir por tanto cosas como las que ha dicho usted esta mañana en la tribuna de que todos aprobamos

sabe usted que eso es falso sabe usted que el gobierno vasco presentó un cálculo de ingresos distinto y que se abstuvo en la votación del cálculo de ingresos como consta también

eso es enredar también y me parece muy bien que usted mismo

quiera ser ahora como lehendakari muy partidario del acuerdo y yo me felicito por ello no se lo voy a negar entre otras cosas porque nosotros no diremos nunca que un gobierno

ilegítimo pero en cualquier caso le vuelvo a repetir la pregunta cuál ha sido hasta ahora la impronta que usted ha marcado y su contribución al acuerdo la que entendemos nosotros que contribuye a desmantelar en estos presupuestos

la que nos reclama el apoyo a los socialistas para aprobar un presupuesto mientras se carga la enseñanza trilingüe la eskola dos punto cero la estrategia de crónicos

las políticas contra la violencia de género o tantas y tantas políticas la que hace que a día de hoy solo tenga usted garantizados veintisiete de los setenta y cinco votos

yo creo que no nos ha querido escuchar cuando le hemos pedido y le hemos planteado alternativas para cambiar las previsiones de ingresos

más social en cualquier caso cuando se habla de enredos políticos cada cual tiene que ser capaz también de asumir de hacer autocrítica y de llevar aparejado la cuota de responsabilidad que cada uno tiene

en relación a lo que era su primera apelación a la necesidad de entendimiento de acuerdo consensos soy especialmente consciente de que es a mí a la primera persona que representa este gobierno a quien asiste la primera responsabilidad

me pregunta usted por el significado del término enredo político y mire se lo voy a tratar de explicar con un ejemplo porque usted mismo ha caído en el enredo hoy mismo con su intervención con todas las referencias a cosas que ha puesto en mi boca y que yo no dije y sabe usted perfectamente que yo no dije y

y acabó convocándolas ese año cuando llegó el momento de aprobar las directrices presupuestarias el anterior gobierno las aplazó cuatro meses para acabar no aprobándolas

que las ha aprobado en dos meses el anterior gobierno convocó elecciones en agosto y aplazó la celebración del consejo vasco de finanzas hasta que pasaran

antes de la cita con las urnas ese consejo vasco de finanzas con aquel gobierno una disponibilidad presupuestaria para el siguiente gobierno y ahora su partido pretende que aquella disponibilidad aprobada sea superada aquel gobierno que incumplió el límite de déficit en dos mil diez y dos mil once modificó en dos mil doce la constitución para que el siguiente gobierno no lo pudiera superar aunque ahora su partido en ocasiones parece propugnar que sí se pueda superar

hasta que comprobó que la propuesta del nuevo gobierno respetaba esas líneas rojas

que era el del ingreso su partido ya había hablado antes del ingreso lo hizo para criticar la propuesta del consejo vasco de finanzas de febrero que pretendía actualizar el cálculo de ingresos una propuesta que calificaron como trampa contable pero que resulta que dos meses después

ha reclamado también con insistencia una reforma tributaria hasta que recibió una propuesta por escrito momento a partir del cual olvidó la reforma y descubrió que lo importante era la lucha contra el fraude o las conexiones informáticas esa la lucha contra el fraude o esas conexiones

o la falta de medidas de estímulo a la economía real es evidente que para su partido señor pastor lo que es imprescindible en euskadi puede ser prescindible en euskadi señor pastor
qué es el enredo político usted me lo pregunta eskerrik asko lehendakari jauna

gracias presidenta señor erkoreka el quince de enero se publicó en el boletín oficial la adjudicación de unos seminarios para la formación bilingüe de los trabajadores de los departamentos y organismos autónomos de la administración dotados con

upyd preguntó por el contenido de estos seminarios y en la respuesta el gobierno vasco concretó que se van a beneficiar de los mismos trescientos cincuenta funcionarios

sorpresa ya que haciendo una simple división resulta que el coste por persona es de casi dos mil novecientos euros

cuando el propio gobierno informa que cada seminario es de veinticuatro horas entre horas de clase

y tutoría individual cada seminario consiste en seis horas de tutoría individual y dieciocho horas de curso en grupo es decir

estamos hablando de trescientos cincuenta personas y estamos hablando de un coste de

por persona lo cierto es que los profesores de inglés se están cobrando aproximadamente veinte euros la hora por lo tanto en nuestra opinión

nos parece un coste desmesurado en cualquier circunstancia pero especialmente ahora en época de crisis por muy especializada que sea la materia y por eso le preguntamos sobre

se justifica el elevado coste que representa el contrato administrativo para la actividad bilingüe para la formación de los trabajadores del gobierno vasco

en cada trabajador por un curso de reciclaje lingüístico de un trimestre de duración de veinticuatro horas de clase cree qué es razonable destinar

para esto gracias señor consejero eskerrik asko maneiro jaunak jaurlaritzaren

señor maneiro no hace falta ser un experto en el ámbito de la metodología del trabajo científico

alcanza inexorablemente conclusiones equivocadas esto lo repetía

conocimiento popular premisas falsas conclusiones equivocadas y es lo que ocurre con su pregunta de hoy que usted da por supuesto una serie de datos que no se corresponden con la realidad y de ahí extrae conclusiones que

de poco plausibles premisas falsas si quiere se las identifico primero en su pregunta en la escrita hoy no la ha reproducido pero en su escrito da por supuesto que el precio de licitación en

es una curiosidad no sé si es una curiosidad o no el hecho de que en un contrato administrativo el precio de licitación coincide con el precio de adjudicación lo que ocurre en este caso es que esa coincidencia no se da el precio de licitación como así se recoge expresamente en el pliego de cláusulas técnicas del contrato era de cien euros por hora y el precio de adjudicación se sitúa un quince por ciento por debajo es de ochenta y cinco por ciento la hora

usted creo que confunde el dinero presupuestado para el programa el total de lo presupuestado por el programa que efectivamente

de lo que va a ser el gasto realmente invertido en la ejecución del programa

pero que se situaran notablemente por debajo hay que distinguir el precio máximo del programa

presupuestariamente para responder al programa y el gasto realmente efectivo es como

euros en el bolsillo para los gastos que puedan surgir se tomara un café volviera a casa y alguien pensara que cómo ha pagado

ha pagado lo que correspondía por el café no los quinientos euros con los que salió a la calle esa es la confusión en la que incurre usted muchas gracias

sí gracias señor consejero en todo caso estaríamos hablando de lo que nosotros consideramos un dispendio de dinero público así es efectivamente puede que sean finalmente ochenta y cinco euros la hora cuando los profesores de inglés cobran aproximadamente veinte euros

si se sabe y cuánto calcula usted que puede suponer en todo caso

ejemplo pero muy gráfico de lo que ha venido ocurriendo en euskadi en los últimos años y que sigue ocurriendo es un simple ejemplo a qué se ha destinado el dinero público durante las últimas décadas efectivamente podríamos haber analizado otro tipo de partidas presupuestarias que se han destinado

otro tipo de partidas presupuestarias que están incluidas en este proyecto de presupuestos y la conclusión en todo caso siempre es la misma y es que siempre hay dinero para el fomento

hay dinero mientras se recortan en otros asuntos absolutamente fundamentales y este es el fondo de la cuestión y esta es la realidad de lo que ha ocurrido en euskadi y sigue ocurriendo y esto es ciertamente así

según ustedes en educación se puede recortar en sanidad se puede recortar en ayudas sociales se puede recortar como hemos preguntado antes al respecto

en comercio en todo eso se puede recortar pero en euskadi siempre hay dinero para el fomento y el uso y la normalización lingüística del euskera esta es la realidad y esta es nuestra queja y esto es lo que también debe decirse en el parlamento vasco y nosotros

por ello porque insisto consideramos que en estos momentos

es un dispendio de dinero público dedicar tanta cantidad de dinero para el fomento y el uso del euskera
cuando los resultados obtenidos realmente son ciertamente lamentables gracias eskerrik asko maneiro jauna jaurlaritzaren

señor maneiro me hubiese podido ahorrar todas las respuestas si empieza por ahí diciéndome

hágase lo que se haga y dígase lo que se diga pero bien como usted me pregunta por lo que va a costar efectivamente el programa le he anticipado en la primera parte de mi respuesta que esto todavía no se puede saber pero podemos hacer una proyección fíjese lo facturado hasta ahora en enero ha sido cincuenta y dos mil novecientos setenta y seis euros en febrero cincuenta y cinco mil novecientos treinta

si proyectamos esto hacia nueve meses nos sale cuatrocientos setenta y cinco mil setecientos dos para el año dos mil trece a lo cual si sumamos

no llega a la mitad del millón de euros al que usted hacía referencia por tanto fíjese estamos operando con unas cifras que se sitúan por debajo de la mitad

si me dice que no le gusta que se invierta un solo céntimo de euro en euskera pues bueno entonces todo lo demás

estamos ante un programa que más que un gasto es una inversión estamos capacitando lingüísticamente a los empleados públicos para que puedan a medio o largo plazo desempeñar sus labores técnicas

en euskera indistintamente o en castellano de manera que

puedan ir desarrollando todas esas actividades con un nivel lingüístico técnico de una

podamos ir suplantando la labor de los traductores

suponen un coste no desdeñable también para el trabajo es por tanto una inversión y no un gasto

lópez de ocariz andrea zurea da hitza buenos días gracias señora
presidenta señora consejera señor lehendakari

en referencia a los propósitos de su gobierno para la elaboración del programa de desarrollo rural dos mil catorce dos mil veinte una vez que contamos con el acuerdo marco financiero plurianual en lo referente a la política agraria común dos mil catorce dos mil veinte que por cierto podemos calificarla de éxito del ministro arias cañete y de su equipo negociador en bruselas éxito porque

inicial de la comisión de reducción del presupuesto para la política agraria común hoy podemos decir que la participación de la agricultura en el presupuesto general comunitario ha subido al treinta y nueve por ciento respecto al treinta y siete por ciento de la propuesta inicial de la comisión y esto ha sido posible gracias al intenso trabajo de la delegación del gobierno de españa y la alianza con los estados de francia e irlanda para conseguir mayor financiación para la agricultura frente a estados que pedían mayor reducción presupuestaria según los datos de la comisión europea españa va a recibir en concepto de ayudas directas treinta y cinco mil setecientos cinco millónes de euros

una mejora de cero coma ocho por ciento respecto al marco financiero en vigor mientras que para el desarrollo rural españa va a disponer

anterior por lo que seguimos siendo el segundo país perceptor de ayudas después de francia todo esto además dentro de una europa de veintiocho estados miembros ay que acordarse que se ha incorporado croacia y con estados que en el anterior periodo estaban en un periodo transitorio y en este periodo van a entrar perceptores a velocidad de crucero por lo tanto estos datos superan

hacía en la que nos dábamos por satisfechos si se mantenía la misma financiación

por lo tanto como les decía satisfacción en cuanto al marco financiero buena negociación del gobierno de españa

además del marco financiero se han acordado algunos aspectos importantes en la gestión de la política agraria común

de acuerdo con la interpelación tendremos oportunidad de hablar del primer plan en otra ocasión en el desarrollo rural los estados miembros van a disponer de mayor flexibilidad para transferir fondos entre el primer y segundo pilar hasta un quince por ciento en ambos sentidos y en el caso de españa hasta un veinticinco

se establece también el incremento de cofinanciación en un tres por ciento para regiones intermedias y más desarrolladas pasando del sesenta al sesenta y tres y del cincuenta al cincuenta y tres respectivamente

se han aprobado otros mecanismos de flexibilidad en la gestión que aunque nos hubiese gustado más amplitud son bienvenidos

para preparar la nueva programación llega el trabajo más farragoso y complicado cómo aplicamos esta reforma en españa

una estrategia que permita afrontar los desafíos estructurales que condicionan el logro de un nivel de vida digno en el medio rural y en definitiva su sostenibilidad por ello desde el ministerio se plantearon

rural mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural

y fijar la población en el medio rural incentivar la innovación y el emprendimiento en el medio rural mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaría

mejorar la internacionalización de las empresas del medio rural optimizar el proceso de cohesión económica social y territorial promover la unidad de mercado en españa

en toda españa es necesario hacer un esfuerzo de análisis y de toma de decisiones que permitan el óptimo aprovechamiento de los recursos económicos y humanos

de los procedimientos para agilizar el cumplimiento de los objetivos y la llegada de los recursos a los beneficiarios finales además están las condicionalidades ante que los estados miembros deben cumplir al inicio y que pueden ser determinantes a la hora de recibir determinados fondos usted sabe señora consejera que la comisión

no solo en la convergencia entre estados sino que también dentro de los propios estados se busca la convergencia entre productores y las actividades del medio rural desde el grupo popular queremos que nos explique cuál va a ser la propuesta que va a hacer en la conferencia sectorial ue creo que va a ser la próxima semana

también nos gustaría saber con quién ha consensuado su propuesta señora consejera desde el grupo popular lo hemos dicho ya en anteriores ocasiones la programación del desarrollo rural que se ha hecho hasta ahora en el país vasco

de el grupo del partido nacionalista vasco contiene pocos criterios objetivos

demasiados criterios políticos esto lo llevamos diciendo muchos años y éramos casi los únicos hoy dos mil trece es todo el sector el que opina en este sentido por lo tanto me gustaría que atendiesen de manera

importante las peticiones que el sector les están haciendo no cumple el objetivo básico del segundo pilar de la política agraria común que se nutre de fondos del primer

es generar actividades económicas en el medio rural complementarias a las actividades agrícolas ganaderas forestales con el objetivo

desarrollo rural del país vasco a día de hoy llegan en un porcentaje

estamos utilizando el desarrollo rural como una política sustitutiva de otros departamentos del gobierno lo mismo reformamos centros de salud hacemos haurreskolas o proyectos municipales institucionales o públicos y basta con darse un repaso por el boletín y podemos ver no hace mucho el listado de ayudas leader por ejemplo

sectoriales hay y cuántos proyectos públicos hay y qué

a los proyectos privados y en un porcentaje muy bajo de toda la programación

reciben cantidades importantes para el desarrollo rural solo porque no están considerados como núcleos urbanos porque el número de habitantes es bajo esto no es el objetivo de la programa del desarrollo rural

claramente y además podemos comparar con zonas de españa

donde la iniciativa privada está siendo apoyada y está generando economías complementarias a la actividad agrícola ganadero forestal hay varios espectros que mejorar en la programación del desarrollo rural

alimentaria y efectivamente también hemos denunciado en esta cámara casos llamativos de ayudas sin

señora consejera estamos ante la elaboración de la estrategia de desarrollo rural hasta el dos mil veinte muy laboriosa pero apasionante porque tiene usted en su mano fijar los ejes y medidas para que las políticas de desarrollo rural se rijan por criterios objetivos que vayan y repercutan en los agricultores en los

su actividad en el ámbito rural por esto señora consejera desde el grupo popular queremos saber

que tiene su gobierno para la elaboración del programa del desarrollo rural dos mil catorce dos mil veinte

que su idea es tener su propio programa del desarrollo rural nosotros compartimos eso no importa lo que importa es los objetivos y en qué los basa y si van a ser

algo que ustedes hasta hoy lo han hecho de manera insistente y creemos que no es el objetivo

medida que pone bruselas convergencia entre productores del estado miembro sí que es importante y entendemos deben de hacer ustedes un esfuerzo importante porque les gusta ir a otro aire y
negativamente en el sector ganadero en el sector agrícola y en el sector forestal eskerrik asko lópez de

jardunari hori ezinbestekoa baita en este sentido sí me gustaría comentarle las directrices estratégicas que vamos a seguir para la elaboración de este plan en primer lugar

y su papel en la cadena agroalimentaria para incrementar su valor añadido si queremos mantener una euskadi agrosostenible debemos apostar decididamente

soportado por explotaciones que sean viables vertebradas en la cadena de valor competitivas demandadoras además de servicios a la administración

aunque en algunos casos como en cualquier otro sector necesitadas de apoyo público para afrontar cierta calidad de inversiones transferencia tecnológica investigación aplicada

como en cualquier otro aspecto del mercado dicho esto es preciso también creer que el sector agrario vasco puede crear de verdad valor añadido y en eso creo que estamos de acuerdo

creo además y estamos firmemente convencidos en el departamento

reforzar la capacidad de negociación en la cadena alimentaria

por una parte potenciar las variables competitivas más representativas de cada subsector y además hacer una correcta selección de los mercados a los que vamos a atender

el desarrollo y creación de empresas agroalimentarias y la diversificación de empresas en el medio rural el sector agroalimentario vasco viene

tanto en la articulación y sostenibilidad económica de nuestro sector productor como en el mantenimiento de un sector rural que es vivo y además activo en toda euskadi

todo este sector en rioja alavesa pero además

este sector en euskadi ha demostrado ser uno de los más dinámicos en la economía vasca con un crecimiento continuado en inversiones y uno de los que mejor está resistiendo además

que debemos también apostar por él y que debemos apoyar tanto en el desarrollo del entramado empresarial

o en la creación de nuevos proyectos innovadores para apoyándonos en nuestros centros tecnológicos que tenemos además específicamente dedicados a ellos

debemos atender a nuestro juicio en especial el papel de la mujer rural debemos buscar una mayor diversificación económica que genere empleo fije población

este ámbito rural la tercera línea estratégica es la de corregir los déficit

productor agrario es obvio como en cualquier otros sector que el envejecimiento está causando

la pérdida de la actividad agraria y del uso del suelo fundamentalmente ligado a explotaciones quizá más marginales por dificultades orográficas

en este sentido el impulso al relevo generacional la reestructuración de las explotaciones marginales el fomento del suelo agrario la formación y el asesoramiento el reforzamiento de la mujer agricultora todos estos aspectos deben figurar entre los principales contenidos nuevo plan de desarrollo rural en cuarto lugar potenciar la sostenibilidad medioambiental del sector este sector agrario

disfunciones medioambientales como pueden ser excesos de fertilizantes la erosión que se produce en todas las matarrasas razones de monocultivos forestales ha habido recientemente distintos tipos de problemas que se han ido corrigiendo de forma paulatina

y las ayudas agroambientales y forestales pero es un sector que desde luego me gustaría comentar que es un sector muy activo y muy proactivo medioambientalmente y que debemos contribuir a que así siga siendo porque

del que gozamos en este momento y además hace que tengamos una gestión sostenible e inteligente de nuestro medioambiente no obstante debemos seguir conjugando políticas ambientales que ya se han venido impulsando hasta ahora y por otra parte con

artificiosamente los costes productivos de nuestro sector agrario que estas nuevas medidas medioambientales no supongan un costo añadido sino que entren dentro de toda la viabilidad económica de nuestro sector agrario por tanto deberemos trabajar en aspectos tales como

el desarrollo y la selección de ayudas medioambientales en esta nueva pac

y por último debemos abordar sin duda la mejora de la gobernanza en el sector como usted bien conoce la conjunción competencial en materia agraria

conlleva cuatro instituciones diferentes tres diputaciones forales y el gobierno vasco en una tarea compleja no exenta de disfunciones

además la gestión administrativa de expedientes el papel y la coordinación de entidades y sociedades al servicio del sector o la burocracia asociada al agricultor y empresa a la hora de canalizar las ayudas

y se han caracterizado hasta ahora por inercias de funcionamiento que rehuyen de un análisis organizativo más riguroso por otra parte se impone la necesidad cada vez más acuciante de una administración transparente y que busque procesos participativos en la toma de decisiones y es este un eje en el que queremos trabajar desde luego a la hora de elaborar este plan

porque he visto algún documento por ahí reciente donde se arrogan ustedes las plenas competencias y me parece que hay que reconocer a cada uno lo que le corresponde por eso me alegra que usted lo diga aquí en cámara

también me alegra oírle que va a hacer una que su estrategia va a ser participativa y que va a contar con los sectores decirle que los sectores del sector primario y del medio rural

las medidas y cómo y qué es aquello que les puede beneficiar y dónde hay errores que hay que corregir y a mí me gustaría que tengan en cuenta sus peticiones porque la experiencia la tienen ellos muy próxima por lo tanto me alegra

con la participación de los sectores y espero que cumpla lo que ha dicho hablaba usted que van a fijar su programación en todos aquellos proyectos que generen empleo comparto pero es que

y otra es generar empleo en el medio rural que no siempre es así porque mire si vamos al proyecto de desarrollo rural que está en vigor

inicialmente lo que hacemos es poner unos técnicos

son proyectos del medio rural pero eso no es lo mismo que generar empleo en el medio rural y además como le decía el objetivo del desarrollo rural es generar economías complementarias actividades económicas complementarias a la actividad agrícola y ganadera porque ya desde bruselas viendo que las exigencias y los reglamentos europeos eran muy comprometedores iban a bajar la renta de las producciones

iban aplicando se consideró que efectivamente había que generar actividades económicas complementarias para desarrollar en el ámbito rural a la actividad

generar empleo sí en el ámbito rural y próximos a las actividades del medio rural propias como son las actividades agrícolas y ganaderas forestales hablaba de sector orientado al mercado y efectivamente

y es algo que desde la comisión están insistiendo mucho de la convergencia de no solo entre estados miembros sino también dentro de los propios estados y efectivamente

agrarias diecisiete aplicaciones cuando tenemos prácticamente un único mercado por lo tanto tenemos que procurar no hacernos entre nosotros y que nuestros productores no salgan mal parados por una mala practica o una mala medida o un porcentaje mal diseñado hablaba de empresas agroalimentarias mire el eje de

agroalimentarias del programa de desarrollo rural dos mil siete dos mil trece se llegó a un veintisiete por ciento

ya venimos haciendo un esfuerzo importante y esto fue una queja muy general en su momento de todo el sector primario y de los productores porque hoy nuestros productores participan muy poco en las industrias agroalimentarias

es muy desligado si estuvieran unidos y ligados estaría bien pero les llegaría pero por hoy no tenemos esa

circulo cerrado por lo tanto estaría bien además que evaluásemos cual ha sido el grado de cumplimiento de ese eje

adaptarse y hacer determinados proyectos para recibir determinados ayudas por lo tanto

y luego bueno pues hay muchos aspectos que mejorar decía la mujer en el ámbito rural

sin ser subvencionados porque mire la mujer en el ámbito rural

hacer de la necesidad virtud y por lo tanto hay muchos proyectos que se han quedado y eso

eskerrik asko presidente anderea en primer lugar comentarle

que el trabajo con las diputaciones forales lo estamos llevando a cabo desde el inicio de la toma de posesión de este gobierno y que

mesa política en la que se encuentran representadas las tres diputaciones con el gobierno vasco donde ha existido además un acuerdo para empezar a trabajar en este sentido y me hacía referencia al inicio de su intervención n el primer turno

un buen presupuesto en europa el problema es que ahora lo tenemos que repartir y cómo lo vamos a repartir porque precisamente en el artículo siete en lo que se refiere a programas de desarrollo rural

permite o establece que los estados miembros podrán presentar bien un programa único para todo el territorio bien un conjunto de programas regionales

y se ha acordado demandar y abrir una negociación con el ministerio es que precisamente ese reparto se haga de forma regionalizada y que se adapte a las necesidades de euskadi en este momento creo que usted decía que diecisiete programas no pero realmente nuestra comunidad autónoma

necesitamos una política muy adaptada a nuestras necesidades en cualquier caso vamos a proseguir con la dinámica de grupos de la que nos hemos dotado hasta ahora focalizando el trabajo que vamos a hacer trabajando desde la eficacia adaptando las medidas al actual periodo de programación a las necesidades del mundo rural desde luego sin ninguna duda y

si no a todo el sector de formas participativas distintas bien a través de

muy desarrolladas ya de de workshops de todo tipo de actividades que nos permita

al sector que le dé la opción de debatir y de aportar propuestas que vayan a ser después incluidas en el plan

comentaba también me decía que el empleo tiene que ir a las zonas rurales creo que le he dicho que lo que pretendemos desde luego es que en nuestras zonas rurales manteniendo empleo se creé empleo fije población y se revitalice el dinamismo y creo que lo he dicho tal como está

que el empleo se creé en las zonas rurales y se mantenga porque eso ayuda a equilibrar el territorio que tenemos

adecuadamente para que sean después sujeto de subvención

necesitan nuestro apoyo también para que esos proyectos se puedan llevar adelante no es que sean poco importantes es que quizá no se han preparado suficientemente y me hace referencia al plan actual dos mil siete dos mil trece evidentemente en el dos mil siete había

creo que ustedes han tenido la posibilidad de modificarlo si no le gustaba vamos en todo caso a ver si este que vamos a preparar a partir del dos mil catorce conseguimos hacerlo

y consiguiendo desde luego que el desarrollo rural que la economía en el mundo rural también sea una prioridad para todos no solo para el gobierno si no para toda la sociedad eskerrik asko

muchas gracias señora presidenta señora consejera vamos a hablar del bec

y por qué estamos como estamos en el año dos mil cinco el gobierno vasco ya antes el gobierno vasco había decidido sustituir la feria de bilbao por lo que hoy

presupuesto inicial de las obras trescientos noventa millónes de euros dos mil cinco

quinientos cuarenta millónes de euros hoy más del doble de lo previsto inicialmente

planteó una proposición no de ley en el que pedíamos

por qué por que ya se veía que aquello no iba bien y en junio de dos mil seis por unanimidad este parlamento y esta cámara

incorporar un plan financiero que financiara esas directrices para ver si se generaba más actividad a la semana siguiente

unca llegó a explicar por qué una feria que se iba a instalar en el bec

como esa feria la dirigía o la llevaba el ministerio de administraciones públicas pues no interesaba que viniera que era tecnimap

volvimos a presentar una proposición no de ley exigiendo que el tribunal vasco de cuentas auditara todo lo que eran las obras y las inversiones

no tuvimos éxito porque el tripartito compuesto en aquel momento por pnv ea e iu digamos que decidió que no que el tribunal vasco de cuentas no tenía que auditar

en julio del dos mil siete hicimos una interpelación preguntando por qué seguían sin presentarse las directrices estratégicas del bec en noviembre de dos mil siete presentamos una moción en este parlamento sobre ese nuevo modelo de gestión para el bec y que se iniciaran la búsqueda de alianzas estratégicas estables para dotar al bec de mayor actividad

en octubre de dos mil ocho preguntamos en este parlamento y en este pleno

alguna actuación para poner fin a la pérdida de dinero público y me quedo aquí en octubre de dos mil ocho porque ahora lo que tenemos ya es un informe del tribunal vasco de cuentas que analiza la gestión dos mil ocho dos mil once y vamos a quedarnos solo en la conclusión porque la conclusión es

os otros son también malos pero bueno el dos mil once es el último y es de lo que partimos pues el resultado de explotación pérdidas más de cinco millónes de euros cinco millónes ochocientos mil gastos financieros dieciséis millónes de euros

cerca de cuarenta millónes de euros al año el costo que nos supone

a todos los vascos con un agravante que es que en estos últimos cuatro años la actividad

ha disminuido y ha disminuido hasta tal punto que tiene

y lo peor de todo es que tiene el setenta y cinco por ciento menos de ingresos de lo que son ferias profesionales o dirigidas a profesionales

los ingresos propios han sido cada vez menores y por lo tanto el gasto que tenemos

se dispara ni que decir tiene que todavía tenemos una deuda viva del bec de más de trescientos cincuenta millónes de euros que habrá que ir pagando

toca hacer algún desembolso bastante importante entonces a la vista de esta situación a la vista de que durante los últimos estoy hablando desde el dos mil seis y estamos en el dos mil trece han pasado pues casi

siete ocho años desde que este grupo se interesó por este tema

no lo veíamos nada claro porque no entendíamos nosotros la necesidad de hacer semejante inversión luego encima se nos reconoció que se habían inflado artificialmente las cifras de la feria de bilbao que decían que es que estaba saturada y necesitábamos otra infraestructura

esto se nos dijo varios años después cuando ya nos habíamos gastado más de cien mil millónes de las antiguas pesetas en esta nueva infraestructura

literalmente un fiasco para todos y por lo tanto nosotros una vez más venimos a este parlamento a preguntar a la señora consejera

tiene este nuevo gobierno vasco con esta infraestructura una infraestructura de ciento cincuenta mil metros cuadrados

y que no está dando ni de lejos los resultados que supuestamente tenía que dar y me quedo aquí

nos proponga algo novedoso si es que lo tiene para intentar que el bec vuelva a ser una feria de muestras omo en su día lo fue por lo menos
un en algunas ferias importantes eskerrik asko damborenea

señor damborenea tal y como usted me decía para poder analizar cómo vamos a analizar el futuro

dar unas cuantas explicaciones previas de lo que ha ocurrido en la financiación de bec en este caso voy a añadir una serie de datos porque parece que nos hemos dado cuenta hoy pero

son desde el inicio son premisas de lo que era el problema

desde el inicio eran dos prestamos uno

que se amortiza de manera gradual desde su obtención y que el calendario de financiación es del año dos mil veintisiete

aportan aproximadamente doce millónes de euros al año esos son los gastos de ese prestamo y por otra parte tenemos un prestamo sindicado por ciento cincuenta millónes de euros del que únicamente se atienden intereses

esas son las premisas de financiación para abordar esta infraestructura

esta información se ha puesto de manifiesto recientemente en ese informe del tribunal de vasco de cuentas públicas pero era conocido desde el principio y es pública

son importes de los prestamos intereses y vencimientos de cada año luego son datos conocidos conocemos también como decía que en dos mil catorce debemos hacer

frente a este prestamo y la previsión inicial era hacerlo con los

que no se han producido innegable pero también con los fondos obtenidos de la venta de los terrenos de la antigua feria internacional de muestras de bilbao

ha existido un consenso institucional para darle otros usos a esos suelos como usted bien conoce que son

por tanto no se han producido ni unos ingresos ni otros y tenemos que abordar

atendemos ese prestamo si bien el esquema de financiación se mantiene hasta ahora porque no se ha modificado no podemos atender ese pago en el año dos mil catorce

conocedor de este hecho ya puso en marcha que habría que atender que habría que

en el año dos mil once representantes de la diputación foral de bizkaia del gobierno vasco de la bbk en aquel momento y del propio bec analizaron diferentes opciones para

e hicieron dos simulaciones a ese respecto por una parte hacer que ese prestamo de ciento cincuenta millónes ese prestamo sindicado

u optar por un periodo de amortización todavía más duradero para que el desembolso anual de las instituciones fuese menor

lo soportan después de realizado este análisis

los participantes en la reunión se emplazaron

se tomara la decisión oportuna y se comenzara el proceso de renegociación

de marzo y en el mismo se decidió que se reiniciara la renegociación de la deuda

que ya estaba operando previamente formada por

una representante n este caso del gobierno vasco del departamento de economía y hacienda un representante de la diputación foral de bizkaia un representante del consejo de administración n este caso

con el compromiso en este momento de buscar esa refinanciación dicho esto qué intenciones tiene el gobierno en este momento

el despliegue de este nuevo modelo que como le decía no es precisamente novedoso pero creo que tenemos que atacarlo permitirá reducir los gastos operativos del bec por una parte a corto plazo

hasta alcanzar progresivamente un equilibrio que no se va a alcanzar ni este año ni el siguiente sino que preveemos que con este tipo de acciones podamos alcanzarlo en el dos mil dieciséis y podremos además incrementar y maximizar el impacto del propio bec en el entorno

el despliegue de este modelo que contemple una paulatina recuperación de la actividad y que en el horizonte dos mil quince dos mil dieciséis haga cuando menos que se produzca una recuperación económica y

muchas gracias señora presidenta pues tiene razón la señora consejera

que nos ha hecho porque

es evidente que si no tenemos dinero para pagar los ciento cincuenta millónes de euros pues habrá que renegociarlos de alguna forma o buscar

deduzco por su comentario y el acuerdo que nos ha explicado de veintiuno de marzo pasado del bec pues que la decisión no es buscar

dilatar el pago en el tiempo o aplazarlo

y en cuanto al plan de competitividad pues nos ha dicho que evidentemente no es novedoso

que van a empezar a ponerse en contacto con otras ferias con nuevos sectores para tratar de traer nuevas ferias nuevos negocios

porque la pregunta que me tengo que hacer es después de diez años absolutos de fracaso qué demonios hacían los que estaban gestionando eso es decir

desde esta tribuna desde este parlamento y además por unanimidad de todos los grupos

que el plan de choque consista en vamos a empezar a movernos vamos a ponernos en contacto con otras ferias vamos a ver los nuevos sectores emergentes

se suponía que esto estaba hecho ahora si no se ha hecho

yo le voy a decir una cosa me ha parecido bien porque es la primera vez que le oigo a alguien de algún gobierno vasco perteneciente al gobierno vasco que diga que hay que valorizar los terrenos que tenemos que repito son más de ciento cincuenta mil metros cuadrados muertos de risa

incluso yo si quiere le puedo aportar ideas es decir yo no sé si las instituciones públicas necesitan tener

cuando no ocupamos en el mejor de los casos un tercio de los mismos a lo mejor este gobierno se tendría que estar planteando vamos a vender algunos módulos o vamos a alquilar módulos

que puedan guardar y que lo utilicen de alguna forma y que por lo tanto tengamos algún ingresos y que cada año no nos cueste

cada vez más dinero simplemente mantener una estructura

el doble por metro cuadrado de lo que costó la ampliación de ifema por ejemplo

en un negocio normal cuando estás pagando el doble de lo que se paga cuando compites con otras ferias pero bueno eso como ya se ha hecho y el problema que lo tenemos es hoy

e incluso de ver la utilidad de la propia feria porque claro si la joya de la corona que era la bienal de la máquina herramienta

hoy prácticamente estamos en la mitad de expositores de los que teníamos hace cuatro años

en todos los sectores incluso en esa bienal por eso los mayores ingresos

derivados de la propia actividad ferial dirigida a profesionales que era lo que era el negocio

nosotros sí estamos por la labor de que esta infraestructura deje de costarnos tanto dinero al año desde luego este gobierno tendrá nuestro apoyo

y lo que le décimos es que no descarte que a lo mejor nos sobran muchos metros de esa infraestructura y a lo mejor pueden tener una utilidad o un valor mayor para el resto de actividades económicas

señor damborenea tal como comentaba en la última parte y usted me decía qué pasa que hasta ahora no hemos trabajado en colaborar con otras ferias y demás pues sí lo hemos hecho sí lo hemos hecho evidentemente y lo han hecho los anteriores gestores

por hacer referencia al último año se ha trabajado intensamente en la búsqueda atracción y promoción de nuevos eventos feriales

a la actividad vamos a decir más tradicional más ligada a la industria más pesada

luego observando ese problema se ha buscado otro tipo de eventos y otro tipo

un trabajo cuyo esfuerzo ha comenzado ya a dar frutos y le voy a poner algunos ejemplos

que ha sido el primer o el principal evento congresual y expositivo del sector aeronáutico estatal imaginenano que precisamente se inaugura el próximo día veintitrés

que es una feria muy importante la más importante de europa en nanociencias y nanotecnología es una feria novedosa en un sector realmente

la feria de maquinaria de ocasión y de biocultura dirigida al gran público no tanto a profesionales o una feria como la de biospain del año pasado también en un sector muy importante que nos permitió colocarnos en el mapa y que parece que puede volverse a repetir es decir se ha realizado una serie de actividades y ahí tenemos

convenios con otro tipo de ferias lo que nos estamos planteando es no hacer nada que no se haya hecho sino dirigirnos a otros mercados y a otro tipo

el actual la actividad ferial ha descendido no solo en bec y en bilbao y en euskadi sino que ha descendido en todo el mundo las ferias dirigidas a profesionales son de otra forma

a las necesidades tanto de los profesionales como a los sectores a los que nos tenemos que dirigir esa es un poco la diferenciación que tenemos que hacer y como usted bien decía desde luego

que hemos acordado y que hemos puesto en marcha es no solamente atender a ferias sino utilizar esos espacios

ligadas a sectores importantes sectores de futuro en euskadi que ya se están desarrollando y que pueden ofrecer además

sin embargo sí me gustaría romper una lanza en ese sentido y decir

una muy importante infraestructura dirigida a mejorar la competitividad y el desarrollo económico del país y que desde luego en nuestras manos está aprovecharlo al máximo y ponerlo en el centro de lo que puede ser los eventos feriales y los ámbitos feriales de europa estamos ubicados

otro tipo de actividades otro tipo de ferias que quizá hasta ahora no nos hemos dirigido a ellas porque estábamos

quizá otro tipo de actividades también nos puedan ayudar a que esto sea viable ese es nuestro plan creo que vamos a poderlo llevar cabo y que desde luego dos mil quince dos mil dieciséis podemos
llegar a un equilibrio económico en bec eskerrik asko eskerrik asko

el pleno del parlamento vasco en la sesión celebrada el veintiuno de febrero del dos mil trece aprobó un texto sobre los trabajos en beneficio de la comunidad a raíz de una proposición no de ley presentada por el grupo popular

un estudio que permita identificar ámbitos de actividad en beneficio de la comunidad para la puesta en marcha de este artículo

en unas recientes declaraciones el consejero de empleo y políticas sociales señaló que veía muy difícil establecer un catálogo de trabajos comunitarios y que tiene muchas complicaciones queremos saber señor consejero qué motivos le han llevado
a analizar dichas declaraciones antes de realizar y remitir el estudio encargado al parlamento vasco eskerrik asko garrido andrea

no fueron tales sino fue una intervención mía en el veinticinco

en la cual una periodista de un medio de comunicación seguramente con su mejor voluntad intentó

por escrito creo que sin entender correctamente cuál fue el contenido exacto de mi intervención

mi intervención la realicé por el mismo motivo por el que el grupo nacionalista presentó una enmienda a la proposición

que fue apoyada transaccionada tanto por el grupo popular como por el grupo socialista porque creemos que es complejo llevar a la práctica lo que es una previsión legal creo que además este planteamiento quedó patente en el debate

especiales para las que habría que estar disponibles y es complejo establecer qué actividades podrían desarrollar sin suplantar el empleo normalizado es lo único que yo trasladé es una opinión que entiendo tengo pleno derecho a expresar si así se me pregunta que además es la que justifica precisamente el encargo del estudio sino no encargaríamos un estudio no estaríamos haciendo un buen uso de los fondos públicos y que no suple ni adelanta ni condiciona

que se conocerá evidentemente cuando concluya eskerrik asko aburto jauna garrido andrea zurea da hitza

sí gracias señora presidenta gracias consejero por sus

en cualquier caso decirle que son declaraciones que aparecen entrecomilladas que en su momento no fueron desmentidas y yo le agradezco la precisión o la matización no sé si ya hay que entenderla como una rectificación pero tengo que decirle que nos sorprendió

en primer lugar como usted bien ha dicho el texto fue aprobado por la mayoría de la cámara concretamente por tres grupos partido nacionalista vasco psoe

de que se cumplan las previsiones legales y fue el objeto de la iniciativa

este artículo la introducción de esta previsión establece la obligatoriedad de que los perceptores de ayudas sociales se mantengan disponibles para la realización de trabajos en beneficio de la comunidad a raíz de la presentación de la iniciativa en concreto por este grupo se llegó a un acuerdo en el que se insta al gobierno vasco a realizar

remitido en el plazo de seis meses a esta cámara para identificar posibles ámbitos

esta previsión como usted también sabe señor consejero la introducción de esta cuestión se realizó en consonancia con la normativa ya existente en algunos países los países más avanzados entorno y nos sorprendió porque este mandato parlamentario como he dicho establecía realizar el estudio en torno a este asunto

del veintiuno de febrero de este año en donde digo que se establecía ese plazo de seis meses y las declaraciones que usted realizó fue a los pocos días

hecho esta pregunta pues no da la suficiente relevancia o la relevancia que se merece a un acuerdo parlamentario y parece que se ha dejado llevar por su propia opinión o por una opinión subjetiva pero entenderá conmigo que este acuerdo desmerece el debido respeto y que aconsejaría pues ser más prudente

futuras yo en cualquier caso le agradezco la precisión y la matización a sus declaraciones iniciales nada más muchas gracias eskerrik asko garrido anderea eta erantzuteko jaurlaritzaren

bai eskerrik asko berriro quiero dejar fuera de cualquier margen de duda mi absoluto respeto

dicho esto no obstante creo que tengo perfecto derecho a expresar la opinión que tiene el departamento de empleo y políticas sociales a este respecto

el espíritu de aquel debate no hay que rectificar

a una periodista que nos reveló que no entendía nada de todo aquello era difícil hacerle entender lo que uno pretendía decir

a esclarecer el alcance la forma o incluso la posibilidad de aplicación de esta previsión legal no impide que tengamos una preocupación sobre la misma no voy a reabrir el debate sobre las personas perceptoras

medidas es difícil por eso encargamos el estudio y las experiencias tanto con los temas de la objeción de conciencia como con las multas de tráfico

saber que destinos se iban a dar a los fondos para la orientación en el empleo

menores de treinta con baja cualificación personas con riesgo de exclusión usted conoce aquellas preguntas y su contestación de la contestación a la última pregunta

en qué momento se iban a plantear el destino de esos fondos ustedes nos contestan

de la siguiente manera como ha quedado contestado esos fondos ya han sido aplicados durante el ejercicio dos mil doce en todo caso como ya ha quedado también explicado con anterioridad fondos del presupuesto prorrogado o en su caso con cargo al que se apruebe próximamente en el parlamento vasco ya están siendo aplicados en la ejecución de políticas de empleo he sabido que todavía el proyecto de presupuestos no está aprobado

con un presupuesto prorrogado pero es que resulta que a una de las preguntas o al grueso de las preguntas sobre estos destinos ustedes nos dicen

el quince de enero de este año dos mil trece pero correspondiente al presupuesto del dos mil doce donde los tres coma uno millónes del año dos mil doce se minoran de la partida que estaba destinada para dicho concursos y con el importe minorado

al final el dinero destinado a orientación al empleo fue a enjuagar déficit

segunda cosa las partidas del dos mil trece y dos mil catorce se anulan como créditos de compromiso

eran en la misma modificación presupuestaria al anularse en dichas partidas no se destinan a otras partidas diferentes a las iniciales

además al no haber ya partida presupuestaria en el dos mil doce para el tema de orientación la ley de presupuestos no te permite tener crédito comprometido para años futuros en esta partida claro a mí me resultaba un poco difícil de entender

y por lo tanto con fecha quince de febrero en el que el gobierno nos responde amablemente a nuestras preguntas nos dice que está funcionando con presupuesto prorrogado entonces

por tanto la pregunta es en fecha quince de febrero qué políticas de empleo se estaban haciendo que tuvieran necesidad de disponibilidad presupuestaria